el proyecto de ley que se somete ahora al pleno de esta cámara

que participan en actividades públicas culturales deportivas y de ocio asimismo busca el equilibrio entre las distintas sensibilidades derechos y obligaciones de los y las organizadoras de usuarios y usuarias y del resto de las personas que pueden verse

la seguridad y la salud de los y las participantes la comodidad y sostenibilidad ambiental de todos los equipamientos en los que se celebren

eskakizun lehenetsia la ley exige a la organización

las condiciones necesarias para que se desarrollen de forma segura y respeten la convivencia también exige que los espectáculos se adapten a los nuevos usos

también a los nuevos espacios donde se producen y asimismo de ley favorece la iniciativa de las personas emprendedoras para lo que elimina las duplicidades administrativas que afectan a la concesión de los títulos habilitantes

como aspecto claramente novedoso cabe destacar

de estos espectáculos reforzando la seguridad jurídica en algunos aspectos como el del régimen sancionador la ley consta de sesenta y seis artículos

cuatro disposiciones adicionales cinco disposiciones transitorias una derogatoria cuatro disposiciones finales además de un anexo

el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas y también de

el título primero establece el objeto y el ámbito de aplicación de la ley determinando las materias que se excluyen y los espectáculos y actividades que

también se regula el consejo vasco de espectáculos públicos y actividades recreativas como un órgano de coordinación y cooperación interadministrativa y de participación pública

y actividades recreativas comenzando por contemplar el elenco de derechos y deberes de las personas espectadoras

las personas organizadoras e incluso artistas intérpretes ejecutantes y demás personal además uno de los aspectos novedosos

contemplan los derechos de terceras personas aquellas que puedan verse afectadas en sus legítimos intereses se contempla también la participación del voluntariado en los espectáculos y actividades recreativas

recoge una mención expresa a las medidas de protección a la infancia y a la juventud tanto en relación a las salas de fiesta las discotecas los ciberlocales

como también en relación a la permanencia en aquellos establecimientos de venta y consumo de alcohol

regula el régimen de apertura de los establecimientos públicos y de celebración de espectáculos y actividades recreativas simplificando el entramado de licencias exigibles para su apertura corresponde a los municipios el control previo a la apertura de establecimientos públicos pero establece que las autoridades del gobierno vasco podrán

propio de la actividad y siempre y cuando el foro sea superior a setecientos personas en la supervisión que es autonómica en estos casos en los casos de espectáculos y festejos taurinos en el caso de festejos pirotécnicos y también en las pruebas que se realicen en las vías interurbanas y la intervención de la autoridad

el aforo sea mayor de setecientos personas incluso en aquellos espacios que sean abiertos pero que estén acotados con restricción de acceso

regula la vigilancia y la inspección también el control en primer lugar establece los casos de suspensión y prohibición legal

porque no se reúnen las condiciones de seguridad suficientes o por la existencia de un peligro cierto para las personas y bienes o

para reforzar la seguridad del público asistente se trataría de eventos de concurrencia multitudinaria en los que la gran afluencia de público o bien porque hubiera antecedentes de disturbios hechos violentos u otras causas extraordinarias exigieran la presencia de dispositivos policiales especiales

cuando los eventos que requieran estos dispositivos especiales beneficien particularmente a los organizadores

esta prestación de servicios extraordinarios de protección policial en espectáculos multitudinarios estará sujeta siempre a la evaluación previa del riesgo previsible

las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro entendiéndose como tales las fundaciones las asociaciones declaradas de utilidad pública

fines de interés general y destinen los ingresos que obtengan al cumplimiento de los fines estatutarios y del objeto de la entidad el título

los tipos de sanciones el régimen de prescripción y caducidad y la competencia y procedimiento

esta nueva ley de espectáculos este proyecto de ley que presentamos hoy de espectáculos públicos y actividades recreativas es un proyecto de ley

actualizada adaptada a los tiempos y a la sociedad vasca de hoy y garantiza el equilibrio entre los derechos e intereses de las personas espectadoras de las organizaciones y de los terceros

entiendo que será un instrumento válido para la regulación eficaz del sector del espectáculo durante los próximos años como también lo ha venido siendo la ley a la que va a sustituir el texto resultante se ha visto enriquecido y mejorado por las aportaciones de todos los grupos parlamentarios

disposición de todos y todas para llegar a acuerdos la valoración positiva de esta cámara será el mejor indicador de la importancia que tiene llegar a acuerdos para el bien de la sociedad

para decir que estando básicamente de acuerdo con el proyecto de ley que presentó el gobierno únicamente presentamos parciales una de ellas fue asumida y quedan vivas otras tres estas tres hacen referencia o tenían como objetivo defender más y mejor la dignidad de las víctimas del terrorismo se debatieron en comisión

en el turno que hoy nos ocupa únicamente las doy por defendidas ya digo que el objetivo era ese defender

a las víctimas del terrorismo por lo demás estamos básicamente de acuerdo con lo que se proponía por parte del gobierno y también con el texto que finalmente salió
de la comisión gracias eskerrik asko maneiro jauna
norbaitek aurkako txandan parte hartu nahi du bai llanos no en contra en contra en el turno en contra zorrilla

exposición en contra de las enmiendas de los dos grupos pero

simplemente manifestar que las enmiendas que ha reservado el señor maneiro para este pleno no las vamos a apoyar porque entendemos que en el proyecto de ley ya se da cobertura ya están defendidas todas las víctimas las del terrorismo también y por tanto

especificidad de ese tema en esta ley besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

ya pone en la exposición de motivos de la ley como ha expresado aquí la señora consejera una de las razones fundamentales de la modificación

veinte años y que evidentemente en estos veinte años transcurridos las costumbres sociales y culturales han variado y las acciones relacionadas con el ocio y ello

una nueva regulación nueva regulación que contempla los derechos y obligaciones como se ha dicho tanto de los organizadores como de los espectadores y de los usuarios así como intenta conjugar las actividades del ocio con el derecho al descanso de los ciudadanos así como con la garantía de la convivencia

venía obligada por la necesidad de adaptarnos a la normativa

y también tiene por objeto la promoción de la cultura facilitando la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas estas fueron las razones como bien se ha dicho aquí para

estamos de acuerdo y lo consideramos adecuado tanto la presentación del mismo como el contenido lo que hicimos fue pedir la comparecencia de una serie

porque considerábamos conveniente que aquellos que pudieran estar vinculados con el objeto de la ley pudieran expresar su parecer o posibles cambios que introducirían al proyecto para mejorarlo así este grupo solicitaba la comparecencia entre otros del sindicato vasco de la policía y

don enrique campo promotor artístico de la federación vasca de consumidores y usuarios

y además de ellos comparecieron también la federación ciclista de bizkaia el delegado sindical del parque de bomberos de donosti y don aritz varela y don sergio regueiro productores de espectáculos a propuesta

bildu desde aquí quiero dar las gracias a todas esas personas que acudieron

a la hora de presentar posibles enmiendas porque fueron comparecencias muy interesantes y que como digo nos sirvieron para el trabajo que realizamos

al proyecto el grupo popular presentó noventa enmiendas de las cuales han sido aceptadas cincuenta y cuatro y estas enmiendas aceptadas iban dirigidas a mejorar técnicamente el texto

a eliminar partes del mismo que estimábamos que eran más propias de un reglamento o que

pretendíamos también dotar de mayor seguridad jurídica de mejorar la aplicación del silencio administrativo de incrementar

no han sido admitidas treinta y uno de esas enmiendas y cinco las hemos retirado algunas de las no admitidas iban dirigidas

de organizador por ejemplo a mejorar la regulación del porcentaje de entradas reservadas al público a mejorar la regulación del derecho de admisión o la necesidad de audiencia previa

o que los competentes para dicha suspensión fueran las autoridades competentes valga la redundancia y no las personas delegadas por ejemplo también

que las sanciones no solo las sanciones muy graves sino también las graves fueran competencia del gobierno vasco su incoación instrucción y resolución del expediente y que en el caso de las muy graves la imposición de la sanción correspondiese al titular del departamento y en el caso de las graves al viceconsejero

a una enmienda que presentamos que ha sido rechazada y que la hemos mantenido y que en caso de que vuelva a no ser

pretendíamos con esta enmienda crear una disposición adicional tercera que regulase los deportes de contacto y a través de esta enmienda lo que pretendíamos

las modalidades de los mismos la protección los derechos de los deportistas regulando las instalaciones equipo arbitral cobertura médica la protección de los derechos del público del organismo regulador y el régimen sancionador

en esta ley y en la ley de espectáculos es porque muchas veces estos eventos aunque pueden ser considerados deportivos también tienen un carácter de espectáculo y en muchos casos se organizan como tal y tienen su origen en la reivindicaciones que aquí hizo

comparecientes que he mencionado con anterioridad y con objetivo sobre todo de dar seguridad a los deportistas y participantes y es que cuando se organiza un evento

se tiene que cumplir una serie de requisitos de controles médicos de seguros pero si se organiza al margen de esta federación como un espectáculo

y a través de una asociación estos requisitos no se cumplen y puede peligrar la seguridad de los participantes porque como digo si se organizan al margen de la federación y la dirección de deportes del gobierno vasco ni juegos y espectáculos tienen base para intervenir por eso

con esta enmienda era eso que se tuviera una base específica para poder intervenir y que cuando se organizase una velada de este tipo sea por la federación sea por una asociación los requisitos fuesen

con las mismas garantías de seguridad con los mismos derechos

tal y como también se ha puesto de manifiesto aquí durante el trámite de la ponencia ha habido una gran receptividad a la admisión de enmiendas de todos los grupos creo que la ley ha mejorado con aportaciones de todos nosotros

favorablemente a todos los artículos salvo a aquellos

sobre los que hemos mantenido enmiendas en los cuales no vamos a votar en contra sino que nos vamos a abstener

consideramos que mejorarían con nuestras enmiendas sin embargo también

que son adecuados y que no merecen un rechazo de plano nada y muchas gracias y por último

turno desearles a todos de verdad una feliz navidad desde el grupo popular y un feliz dos mil dieciséis eskerrik asko llanos andrea erantzuteko

eguerdi on guztioi durante la tramitación de este proyecto de ley de espectáculos públicos y actividades recreativas

de las cuales en ponencia se han aceptado cincuenta y siete y se han transado otras cincuenta y seis es decir que de una

mejorando así el texto resultante con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios brevemente algunos ejemplos de enmiendas aceptadas que creemos que pueden tener relevancia pues serían algunas a propuesta de eh bildu

inicialmente previstas en el artículo treinta y uno para espectáculos ocasionales en fechas concretas que se establecían para garantizar el pago de posibles sanciones de multa a propuesta del grupo socialista la composición del consejo vasco de espectáculos públicos y actividades recreativas se determinará reglamentariamente y su informe será preceptivo también aquí coincidía con el grupo popular otra también es que el silencio administrativo para la autorizaciones

a propuesta de eh bildu upyd y del grupo popular se aclara el tema de las tasas por prestación de servicios especiales de la ertzaintza

son las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro especificando cuales se consideran así en el proyecto he de reconocer que con el grupo socialista y con eh bildu ha sido posible llegar a un grado de consenso total y por ello agradecer a la señora gallastegui y al señor arzuaga

ninguna de sus enmiendas no aceptadas respecto a upyd como he tenido que intervenir con anterioridad no me voy a reiterar

finalmente respecto al grupo popular como bien ha dicho usted señora llanos se han asumido muchas de sus enmiendas concretamente cincuenta y cuatro que como decía antes que junto con las del resto de grupos han mejorado el texto final

se ha reservado para pleno como bien decía las treinta y uno restantes de las enmiendas reservadas muchas plantean modificaciones formales

esencial del proyecto de ley pero que la ponencia consideró que no contribuían a mejorar el texto resultante a diferencia de un número mucho mayor esas cincuenta y cuatro

no vamos a entrar aquí ahora al debate concreto de cada enmienda entendemos que para eso ha estado el trabajo en ponencia

y dado que ha hecho referencia a ello voy a mencionar dos en concreto una la que hacía

del grupo popular que hacían referencia a la determinación de los órganos competentes para sancionar

y eliminar la competencia de la dirección de espectáculos del gobierno vasco no nos parece apropiado en el caso de los ayuntamientos supondría que se quedarían prácticamente sin capacidad sancionadora

incluso en los casos en que los propios ayuntamientos les correspondan la autorización control e inspección y también haré referencia dado que también en comisión y hoy también le ha dado mayor relevancia

una disposición singular para regular los deportes de contacto

de la federación de deportes de contacto entendemos que tal propuesta la planteada por el grupo popular

ni por su contenido ni por su extensión dado que pretende regular aspectos que tienen que ver más con el ordenamiento deportivo que con el de espectáculos como las modalidades deportivas

o los jueces y los árbitros bukatzeko ponentziako

duela al igual que el resto de compañeros felicitarles

de mejora que llevamos marcada besterik gabe eskerrik asko

gracias presidenta buenos días señorías buenos días lehendakari consejeros y consejeras egun on guztioi

e invito a quien quiera a que compare el proyecto remitido en el dos mil doce con el que aprobamos ahora

así que una vez más hemos aprobado a ber mesedez isiltasuna

una norma de clara huella socialista como otras varias como la ley de aprendizaje a lo largo de la vida la de incompatibilidades o la de vivienda

en aprobarla porque en realidad al actual gobierno se le dejó el trabajo muy adelantado pero luego lo enmendó para finalmente la tramitación en esta cámara acabara aceptando nuestras enmiendas que lo dejan prácticamente como en el original remitido por el gobierno socialista

muchísimo la disposición consensuadora la actitud consensuadora del representante del partido

en cuanto al fondo y brevemente señalar que efectivamente cómo lo ha dicho la consejera y algunos otros portavoces que me han precedido

a la normativa comunitaria derivada a la trasposición de la directiva

con el fin de hacer más sencillos los trámites eliminar duplicidades y otorgar seguridad jurídica era necesario también garantizar el equilibrio

y de las empresas para ofertar un amplio y diverso elenco de eventos y todo ello además sin más límite el respeto a las obligaciones legales derivada del interés general por razones de seguridad convivencia y respeto a los derechos de las personas sean estas usuarias organizadoras o terceras afectadas tocaba también efectivamente reforzar la seguridad de los locales públicos garantizando al mismo tiempo

con problemas o capacidades distintas y mejorando los controles y la inspección otorgar asimismo mayor protagonismo a los ayuntamientos en el control previo a la apertura de los establecimientos públicos y también tocaba delimitar las competencias

facilitando las cosas a la ciudadanía y evitando la duplicidad de intervención de las distintas administraciones públicas con esta ley señorías se mejora sustancialmente la relación administración administrados al consagrar como efectivamente ha recordado el señor el silencio administrativo positivo en los procedimientos para la obtención de las autorizaciones

en vía y espacios públicos obligando por tanto a la administración a responder en plazo y también se mejora de manera importante el régimen de vigilancia

de estos espectáculos así como el régimen sancionador dotándole de mayor seguridad jurídica en definitiva señorías

resumiendo aprobamos la ley número diecisiete de esta legislatura excluidas las tres leyes de presupuestos la quinta ley

de diecisiete cinco a iniciativa del ejecutivo y recuerdo este dato muy brevemente porque estamos en los del mandato y si se echa un vistazo hacia atrás

aunque últimamente estamos viendo que se está colapsando un poquito el tráfico sobre todo con tanta remisión y sobre todo con tanto anuncio de proyectos que ya veremos si llegan

hoy una realidad no estará en vigor para

si me permiten voy a aprovechar este último pleno del año para desearles señorías que disfruten

este es un proyecto de ley que lo que básicamente pretende llevar a cabo es introducir una serie de modificaciones técnicas y adaptar la ley de elecciones al parlamento vasco

en relación a los aspectos técnicos digamos que no tengo demasiado que decir todo esto en fin se lo dejo

han conseguido mejorar el proyecto

únicamente cuatro fueron incorporadas finalmente al dictamen pero más allá de los aspectos técnicos y puesto que estamos hablando de una ley electoral

aprovecho para realizar una serie de reivindicaciones que son puramente políticas y de regeneración de la democracia

y no solamente en euskadi sino en el conjunto de españa por lo tanto quiero plantear cuatro propuestas políticas a introducir en esta ley electoral o en la ley electoral nacional y en todas las leyes electorales vigentes creo que son reivindicaciones ciudadanas que durante los últimos tiempos durante los últimos años durante los últimos meses están ganando peso

parlamento en varias ocasiones durante los últimos seis años y también

en el congreso de los diputados en primer lugar consideramos indispensable para garantizar que el voto de cada ciudadano valga igual

la implantación de la circunscripción única tanto para euskadi como para el conjunto de españa y es una

planteamos cuando presentamos en su momento la enmienda a la totalidad evidentemente este es un asunto pendiente y puesto que las elecciones generales fueron este mismo domingo creo que es buen momento para reivindicar ya digo no solamente en euskadi sino en el conjunto de españa la implantación de la circunscripción única

podemos echar la vista a los resultados electorales y comprobar cosas tan absolutamente extrañas e injustas como que izquierda unida con

obtenga dos diputados y el partido nacionalista vasco por ejemplo

obtenga seis aprovecho por lo tanto para reivindicar la implantación de la circunscripción única

sino para el conjunto de españa aprovecho también para reivindicar y es algo que también recogimos en la propia enmienda a la totalidad que presentamos a este proyecto de ley la implantación no ya de las listas desbloqueadas sino de las listas abiertas

a los ciudadanos también esta idea la hemos defendido en este parlamento al menos en dos ocasiones durante los últimos seis años y lo cierto es que todos los partidos políticos votaron en contra y lo mismo ha venido ocurriendo durante los últimos años en el congreso de los diputados es una reivindicación que se

es una reivindicación que se usa mucho y se reivindica en los mítines de determinados partidos políticos pero a la hora de la verdad lo cierto es que nadie lo propone y cuando alguien lo propone como upyd todos los demás partidos políticos votan en contra por lo tanto buen momento también hoy para reivindicar

de las listas abiertas que además es un asunto que está reflejado en una enmienda que se mantiene viva de upyd también reivindico que concejales o alcaldes no puedan ser a la vez parlamentarios vasco creo que el hecho de ser parlamentario vasco exige un trabajo

alcalde o concejal y esta misma idea la defendemos también para el conjunto de españa esta misma idea la he defendido también

y todos los demás partidos políticos votaron en contra y creo también que vía legal aunque no solamente vía legal hay que

que durante los últimos meses se ha dado en españa por parte de determinados partidos políticos hay que habilitar leyes que impidan político que impidan que un cargo público pase de un escaño a otro en apenas unas horas hay que impedir que haya partidos políticos

emendakinak zure emendakina defendatu ez beste gauza estas ideas están perfectamente recogidas en la enmienda hemendik aurrera defendatu zure emendakina bai en la enmienda de totalidad que presentamos

hay que impedir que haya determinados partidos políticos que negocien con cargos públicos de otros partidos políticos para incorporarlos a sus listas este es un tema de mucha actualidad esto ha ocurrido mucho

que estas medidas de regeneración de la democracia se puedan poner en marcha cuanto antes ya digo para regenerar la democracia

envilece y degenera la política evidentemente ya sé que para llevar a cabo estas reformas hay que reformar

como me lo recordarán algunos portavoces en breve pero en todo caso puesto que hablamos de una ley electoral creo que es necesario hablar de política los aspectos técnicos están bien e importan pero creo que los ciudadanos importa sobre todo los asuntos

asuntos políticos de extraordinaria importancia el grupo socialista a través de una enmienda presenta una enmienda que incorpora pretende incorporar las listas

no mejora nada el asunto en lo que se refiere a cómo está la ley actualmente y además de esa forma se imposibilitaría por ejemplo la presencia de tres mujeres

por lo tanto votaremos en contra de esa enmienda socialista que sí efectivamente a diferencia de otras muchas pues es una enmienda que podemos considerar política y digna de ser al menos discutida el cinco de marzo del año dos mil quince hace apenas unos meses

de comunicación en un periódico nacional que el partido socialista defendía la introducción de listas abiertas

pedro sánchez me parece correcto que el partido socialista defienda

mejor que la introducción de listas cremallera ojalá pueda ser posible porque estas reformas y otras muchas de regeneración

son indispensables poner en marcha en el conjunto de españa en los próximos meses ojalá puedan llevarse a cabo ojalá ustedes tengan la valentía
de llevarlas a cabo gracias eskerrik asko maneiro jauna

parlamentarios lehendakari miembros del gobierno buenos días para defender brevemente las enmiendas del partido popular del grupo popular al proyecto de ley de quinta modificación de la ley de elecciones al parlamento vasco nosotros hemos he mantenido para este pleno doce enmiendas de las veintinueve iniciales otras diecisiete enmiendas presentadas han sido aceptadas por transacción o han sido asumidas

de ponencia nosotros hemos querido trabajar sobre el carácter fundamentalmente técnico de esta ley y su necesidad de un mejor

y condicionamientos electorales nuestras enmiendas han tenido como objetivo fundamentalmente la seguridad jurídica y para ello se ha hecho referencia y se ha llevado

por la junta electoral central por la junta electoral vasca por la propia ley orgánica de régimen electoral general

que como legislación de carácter básico debe de tenerse también reflejo en cuenta en la normativa autonómica también otro tipo de circunstancias importantes como las sentencias del tribunal constitucional y nos hemos referido en la justificación de nuestras enmiendas a la sentencia

barra dos mil once que era una referencia importante también para el conjunto de las enmiendas

acuerdos instrucciones adaptaciones condicionantes de la junta electoral central de la junta electoral de la comunidad autónoma del país vasco y fundamentalmente de la legislación básica es lo que ha constituido desde luego

de nuestras enmiendas en este proyecto de ley también hemos tratado de dar claridad a algunas cuestiones confusas y con poca seguridad jurídica como es lo relacionado con los formatos electrónicos en el proceso electoral

la claridad de la ley que es algo fundamental en todas las leyes y lo que seguiremos hablando desde luego en los procesos electorales que tenemos en este parlamento

redactar y de explicar mejor algunas de las cuestiones que se planteaban un tanto confusas esa es nuestra posición

un proyecto de ley que entendíamos fundamentalmente técnico efectivamente

las enmiendas que nosotros mantenemos y entendemos vivas iban a mejorar desde nuestro punto de vista esas cuestiones que tienen que ver con la seguridad jurídica

del proyecto de ley en cualquier caso no han sido asumidas y seguramente serán rechazadas pero bueno ahí están mantenidas y las votaremos a favor y también como hicimos

votaremos en contra de las enmiendas mantenidas por el grupo parlamentario eh bildu y las dos enmiendas mantenidas por el grupo socialista

mantenidas y planteadas por el grupo mixto upyd aprovecho también para felicitarles a todos las pascuas y para desearles un

resulta imprescindible tener unas reglas de juego compartidas y por eso las mejores leyes electorales son las que se elaboran con el mayor consenso posible y esta afortunadamente lo ha tenido gracias a este esfuerzo para tener acuerdos

a su poco lucido bagaje legislativo aunque quiero recordar que este texto que aprobamos hoy

del proyecto de ley homologo elaborado por el anterior gobierno socialista un proyecto que entró en la cámara

que no pudo ser aprobado por falta de tiempo y que hace

si el actual gobierno no hubiera demorado de forma inexplicable su presentación hasta mayo del año pasado porque como he dicho el grueso del trabajo de esta ley de quinta modificación tenía un trabajo ya hecho de antemano sobre todo lo que se refiere a su puesta al día

la loreg pero también para adaptarla a los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad para ampliar los derechos ciudadanos en relación al voto

y para avanzar en los principios de participación de igualdad y de democracia como decía gran parte de las novedades que incorpora la nueva ley

como por ejemplo la prohibición de las candidaturas de difundir propaganda en precampaña electoral la modificación de determinadas causas de inelegibilidad de miembros del parlamento para adaptarlas a las situación actual del sector público de la comunidad autónoma la reducción de los gastos a candidaturas en las elecciones congelando las cuantías de subvenciones públicas para las próximas elecciones

tenemos que ser más austeros y contenidos en los procesos electorales la limitación de la realización por parte de los poderes públicos de campañas institucionales en periodo electoral

y el allanamiento de obstáculos que dificultaban la participación de personas con discapacidad visual o auditiva nuestro grupo parlamentario está satisfecho del trabajo realizado se han incorporado al mismo doce de las catorce enmiendas parciales que presentamos

no es una satisfacción plena aceptamos dejar fuera de la ley la cuestión del voto electrónico ya que es cierto que es una cuestión que requiere previamente una regulación general

y es la mejor forma de dar plenas garantías a unos procedimientos que de forma inevitable se van a imponer

no entendemos que no se haya aceptado la enmienda que presentamos y que mantenemos hasta el día de hoy para hacer real en las candidaturas electorales la igualdad que se predica

no comprendo que si un grupo sostiene que la apuesta por la igualdad es inevitable se niegue luego a que las listas tengan que estar compuestas al cincuenta por ciento

lamento que hayamos perdido la ocasión de que euskadi vuelva a situarse a la cabeza en materia de igualdad y que partidos que presumen de progresistas voten en contra de nuestra enmienda

en la igualdad y como creemos en ella ya la practicamos en nuestras candidaturas que son obligatoriamente en cremallera compuestas por un cincuenta por ciento de mujeres

alternativamente estamos convencidos de que más pronto que tarde

se terminará recogiendo también por ley y entonces algunos quizás lamenten haber perdido la oportunidad de haberlo hecho hoy mismo nada más muchas gracias y como han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra feliz navidad

se hicieron y se han hecho con el objeto de adaptar la ley electoral vasca a la realidad política y social lege proiektu honek aukera

los contenidos del discurso del señor maneiro porque ya lo hicimos en el debate de totalidad hoy se trataba de otro debate

porque ya se lo dijimos entonces algunos o muchos de los aspectos

por lo tanto es verdad que es bueno hablar de política y de asuntos políticos en un parlamento pero pues como decía santa teresa cada momento tiene su afán

en ponencia y en comisiones durante todo este tiempo pasado respecto a las enmiendas que mantiene el partido popular el señor

faciliten o hagan más entendible el texto al contrario siguen la técnica de replicar aspectos ya establecidos normados ya en la legislación básica en la loreg

autonómicas y el proyecto opta por la vía de la remisión a la ley básica en vez de a la réplica porque

y por un aspecto de seguridad también porque cada vez que cambie si no o se produzcan pequeños cambios en la normativa o varíe la jurisprudencia de la junta electoral tendríamos que estar procediendo a la modificación de la ley y esto

votamos en contra de las enmiendas mantenidas respecto a las enmiendas que quedan vivas un poco más de contenido político el señor

identificando igualdad y políticas de igualdad con las listas cremallera me parece una reducción

excesivamente simplista perdóneme la expresión señor creo que hay esuna operación básicamente cosmética creo que tenemos una buena legislación en materia de igualdad evidentemente nuestra ley de igualdad también como todas las leyes requieren evaluación continua y probablemente en su momento también modificaciones pero yo creo que precisamente el sistema que estableció la ley de igualdad que impulso la ley de igualdad

la medida de discriminación positiva de acción positiva que es exigir que por lo menos el cincuenta por ciento en todas las listas por lo menos tiene que estar compuestas por el cincuenta por ciento por lo menos de mujeres por el cincuenta por ciento por lo menos de mujeres

va más allá como medida de acción positiva va más allá que

está bien defender la lista cremallera sobre todo porque el partido socialista ha hecho a nivel del estado de eso

no es más igualitario o no son medidas más proactivas a favor de la igualdad una lista cremallera que la lista que plantea la actual legislación más le voy a decir la legislación actual permite listas exclusivamente de mujeres y de hecho hay tradición en este país me remito por ejemplo

bajo el nombre de plazandreok que son exclusivamente formadas por mujeres y con la propuesta que ustedes hacen esas listas serían imposibles y un partido de corte feminista por ejemplo al que nadie pondría como contrario a la igualdad no podría presentarse porque se les estaría obligando a repartir

y además de manera cremallera como ustedes plantean porque una cosa es la igualdad y otra el igualitarismo y son conceptos distintos

mejor recogido que el planteamiento que hace el partido socialista eh bilduren

y entiendo el planteamiento de defensa

de su planteamiento pero no creo que es acertada el instrumento no es

y el instrumento no es condicionar un derecho fundamental del ciudadano como

lingüística respecto a la ilegibilidad por condena por

porque está recogido en la normativa básica por condena otra cosa en las enmiendas que planteaba el señor maneiro que

la inelegibilidad por condena sino simplemente por la mera imputación

los campeones de la judicialización de la política quienes han presentado un montón de denuncias contra numerosos cargos públicos que han sido absueltos pues estaríamos vulnerando

condicionando un derecho fundamental como es el del sufragio pasivo amaitzeko

y nada más que desearles a todos ustedes a aquellos que han tenido un buen dos mil quince que el dos mil dieciséis sea igual de bueno

además de reivindicar otra vez la implantación de la circunscripción única

además de reivindicar que efectivamente concejales o alcaldes no puedan ser además

y además de reivindicar medidas contundentes para luchar contra esa lacra llamada transfuguismo político efectivamente no he citado otras dos medidas que nosotros planteamos y que creemos que planteamos con toda la razón del mundo en concreto que imputados acusados por corrupción política no puedan ir en listas electorales y que imputados por delitos de terrorismo

me parece una vergüenza absoluta un ejemplo que se ha dado recientemente un acusado por algo que puede calificarse como corrupción política

del partido popular como número dos por segovia resulta que ha estado toda la campaña electoral desaparecido mientras el partido político pp en este caso efectivamente sí le pedía

o mientras periodistas de teda condición trataban de

los últimos diez días de campaña a pesar de que estaba siendo investigado y a día de hoy es diputado nacional esto es una vergüenza absoluta con la que hay que acabar no puede ser que imputados perseguidos por corrupción política se presenten

y mucho menos puede ser que estas personas salgan finalmente elegidas si no puede incorporarse este asunto en la ley lo que hay que exigir a los partidos políticos es que impidan que semejantes personajes puedan llegar a representarnos y esto es una absoluta

no lo he citado pero que quiero citar imputados por corrupción política deberían estar fuera no solamente de las instituciones

de las propias listas electorales que se defiendan que se defiendan ante la justicia ellos solos pero creo que sería una medida de limpieza

que está perfectamente reivindicado por la mayoría de los ciudadanos y que además por cierto algunos de los partidos políticos que permiten estas prácticas luego en determinadas tertulias o debates pues defienden estas prácticas que luego finalmente no se ponen

reivindico acuerdos amplios pero acuerdos amplios no para dejar las cosas como están sino para cambiarlas para regenerar de verdad la política en españa en relación a la enmienda del grupo socialista y las famosas listas cremallera a nosotros nos parece muy correcto que se reivindique la presencia

nos parece correcto ya está perfectamente reflejado en la ley pero lo que nos propone el grupo socialista no es eso sino las listas cremallera lo cual por ejemplo como ya se ha dicho

en la correspondiente lista y esto nos parece que sería un paso atrás mejor en todo caso señor pastor las listas abiertas ustedes las han defendido el secretario general del partido socialista lo ha dicho públicamente pero no se trata

tan interesantes en las tertulias no se trata de decir estas cosas tan interesantes

en campaña no se trata de que nos gobierne la telecracia se trata de que a través del voto parlamentario cambiemos las cosas de verdad y aquí pueden cambiarse esas cosas no en los debates

no en los mítines mentirosos de algunos por la vía de los hechos estas medidas yo las he escuchado defender no solamente a upyd sino sobre todo

a otros partidos políticos muy poderosos listas abiertas lucha contra la corrupción igualdad de voto etcétera etcétera

aplíquenla cómo con su voto eso es la forma de cambiar las cosas y de regenerar la democracia menos marketing y más política feliz navidad y sobre todo

solamente por contestar al señor maneiro decía en su primera intervención que ha presentado batería de iniciativas en muchas ocasiones y que en todas ellas se ha quedado él solo contra todos bien cualquier persona normal

si está equivocado y el señor maneiro sin embargo pertinaz como la sequía en algunos momentos en algunas partes del mundo considera que estamos equivocados todos los demás y que todos los demás incluido la inmensa mayoría de los ciudadanos de euskadi y del estado que estamos equivocados

tiene la razón en todo caso creo que si usted piensa eso tiene muy merecidas y además muy necesitadas esas vacaciones o ese descanso que va a tomar y además

va a descansar mucho más así que con ese deseo muchas gracias a todos y feliz navidad eskerrik asko iturrate jauna

el desempate hacerlo ahora en vez de dejarlo para febrero

ere el parlamento vasco reunido y todos los grupos políticos que lo constituimos queremos mostrar nuestra más absoluta solidaridad con aquellas personas que se ven obligadas a dejar todo lo que tienen en busca de protección

para desarrollar todo su potencial recibiendo un trato igualitario y respetuoso con los derechos humanos y la legalidad

haurren kasuan considera fundamental seguir reforzando las operaciones de búsqueda y rescate en el mediterráneo puesto que salvar las vidas sigue siendo la prioridad en este momento insta al gobierno de españa que a través de todas las vías existentes

una respuesta coordinada y consensuada con los estados miembros para acelerar el proceso de la atención social jurídica y económica a los solicitantes de refugio político en los países de la ue